gracias presidenta mire señor orbegozo no necesito que usted me explique lo que es el perfil del contratante

por cierto criticando toda esta historia ni creo que necesite usted ser zafio a la hora de intervenir porque para defender la posición de uno

en cualquier caso sigo manteniendo íntegramente lo que decía a requerimiento de este grupo el señor consejero nos contestó

los informes requeridos se han remitido algunos es verdad después de esta polémica no todos no ha llegado ningún informe correspondiente ni a la consejería de función pública

y si como ustedes dicen han avanzado tantísimo en transparencia no sé qué problema tiene usted en asumir el compromiso de que ese informe siga llegando como hasta ahora con carácter trimestral

en absoluto porque como le he dicho antes en mi anterior intervención la transparencia de verdad se demuestra cuando hay que dar respuesta a preguntas incómodas no cuando hay que hacer

porque afirmar como hacen ustedes permanentemente que se apuesta por la transparencia activa y por la felicidad universal que es lo que viene a decir su enmienda en este punto no cuesta nada es gratis es lo mismo que nos anunció hace cinco meses ya el señor erkoreka cuando presentó a bombo y platillo ese proyecto al que usted hacía referencia de la ley de administración pública

que la ley estatal porque crea la agencia vasca de transparencia y garantiza el acceso de la ciudadanía a la información pública y eso puede estar muy bien aquí también se ve que una cosa es predicar y otra practicar lo que se dice porque al mismo tiempo que el portavoz del gobierno sacaba pecho anunciando que el proyecto de ley reduce a quince días

de los ciudadanos el mismo consejero de función pública comunicaba

a la información que hasta ahora se venía recibiendo en el parlamento a todos los grupos parlamentarios sobre los contratos menores por cierto

del proyecto de ley de administración pública vasca porque nos parece una mala copia de la normativa estatal y porque no aborda de forma decidida ni la reordenación de la estructura administrativa

porque cómo encaja esa transparencia activa que se anuncia y que ustedes recogen en su enmienda para este punto con el intento de dificultar la labor del parlamento

porque entendemos que solo se pretende esto y si no es así ustedes tienen la perfecta posibilidad en su mano ahora mismo

hasta ahora porque elaborar un informe integrado trimestral integrado digo señor orbegozo de los contratos no da más trabajo que hacer uno anual

por cada uno de los departamentos y creemos que el gobierno se ha retratado con este episodio como en tantos otros y sinceramente pensamos que esto no les va a salir a ustedes gratis salvo que sean capaces por una vez que es un buen ejercicio de rectificar un error y corregirlo

como sucede en otros tantos asuntos donde una cosa es lo que el gobierno publicita y otra muy distinta lo que hace o lo que no hace

ya sabemos que es mucho más fácil gastarse decenas de miles de euros de los contribuyentes en campañas de publicidad para autobombo como la que está en marcha actualmente que no dice nada abordar reformar necesarias que no se abordan y actuar con decisión y con recursos ante los problemas más aguzantes de la sociedad ahí

que ustedes pregonan con hechos no con un sonsonete propagandístico pagado con recursos públicos pues claro que se va a comprometer el ejecutivo con las personas

y detrás de eso que mas hay tiene el gobierno la posibilidad de salir del charco en el que se metió es muy fácil

a la que nos comunicó el señor erkoreka y volver a enviar los informes trimestrales que se enviaban al parlamento y solamente tiene usted que apoyar la enmienda que hemos pactado

anunciado que también apoyará y a los que quiero darles las gracias

que vuelva a remitir trimestralmente a esta cámara los informes sobre los contratos menores que realiza para garantizar tres principios esenciales a nuestro juicio

y de los ciudadanos a los que representamos la transparencia a la que entendemos que está obligada la administración y no hacemos otra cosa que cumplir la función

orbegozo nos habla del registro público de contratos que yo sí me he leído

evidentemente después de buscarlas en internet con estas manitas porque

y buscar la información y también somos conocedores de la asistencia del registro público de contratos pero lo uno no quita

como ciudadanos de esta comunidad podamos acceder ahí pero qué problema hay

mande esa información a este parlamento porque yo ya he entrado a ese registro y hay que poner qué quieres buscar qué tipo de contrato quién es el adjudicatario que sí pero que no tiene nada que ver que no es una cuestión de torpeza

que creo que no hace falta bajar aquí y llamarnos torpes y perezosos

porque yo torpe y perezosa se lo aseguro no soy

y yo busco la información pero creo que no pasa nada porque activamente el gobierno informe a esta cámara de las cosas que realiza es más esta misma semana hemos tenido con la señora gorospe en la comisión de hacienda un tema

y hemos acordado que el gobierno informe a esta cámara de una información

pero que esté en el boletín no quita para que esté en esta cámara informada porque en esta cámara a esta cámara lleva muchísima documentación que está publicada en otras webs en las webs de hacienda por ejemplo que yo personalmente consulto habitualmente

como información a los grupos parlamentarios la cuestión de la ejecución presupuestaria etcétera etcétera por lo tanto

a la ciudadanía por supuesto nosotros los primeros pero de ahí a cerrar la puerta a la información a los parlamentarios y parlamentarias hay un trecho sí se cierra la puerta señor orbegozo porque no quieren traer esa información trimestralmente

si es que la información no hace daño la información no hace daño es mejor para ustedes y mejor para nosotros y mucho mejor para la actividad del gobierno que nosotros parlamentarios y parlamentarias tengamos esa información y podamos entre todos hacer mucho mejor servicio a esta ciudadanía

de lo que se trata lo decía en la primera intervención es de saber si con esta medida del gobierno

a todas luces parece que negativa a todas luces parece que negativa toda la información está publicada realmente toda la información está publicada en diversos documentos en el boletín oficial del estado en el boletín oficial de la comunidad autónoma

todo si diéramos por bueno esas publicaciones

nos podríamos ahorrar las preguntas para respuesta por escrito incluso alguien podría en un

porque se le puede preguntar a un consejero por el pasillo alguien podría decir también

porque podríamos acordar en los despachos propuestas insisto

yo no quiero etiquetar esta decisión del gobierno como un intento de entorpecer nada no quiero lo que sí creo que es un error sí creemos que es un error y los gobiernos

decíamos antes aprobando leyes y dotándonos de herramientas que hoy nos permite

que de otra manera le sería más complejo pero la esencia del parlamentarismo la esencia del parlamentarismo se sustenta también en esa información que los gobiernos de una manera de oficio si me permiten la expresión remiten a los parlamentos para un mejor control

a lo mejor es un engorro para el gobierno y para los departamentos remitir los contratos menores a este parlamento con carácter trimestral pues a lo mejor es un engorro a lo mejor lo es

beneficia a la transparencia y el mejor control de este parlamento sobre la acción del gobierno

que sobraba que es mejor remitir esa información cada tres meses que cada año porque si no para qué se remite cada año que no se remita nunca no tiene sentido es una incoherencia por lo tanto votaremos a favor

rectificará esta orden que lo único que hace es en cualquier caso

que nos podíamos haber ahorrado muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

realmente no hay ningún problema pero es que es absurdo que estemos

y nos empeñemos en que el gobierno vasco tiene que remitir a esta cámara una información que todo el mundo tiene disponible

tres meses dos una semana cuatro meses lo que usted quiera

no estamos hablando aquí de transparencia no es lo que realmente usted pedía en su iniciativa original señor pastor

en esta transaccional usted parte de una afirmación falsa

que le sirva una vez más para atizar a este gobierno es que es lo que está pasando aquí

sobre la limitación de acceso a la información sobre los contratos menores

tanto las preguntas las solicitudes de información como las respuestas el año dos mil trece que se hacía la misma

se responde se remite la relación de contratos menores porque entonces no existía el registro vasco no existía la obligación de publicarlos y luego se remite el resto de la información los contratos menores que están publicados en el perfil del contratante

llegamos al dos mil catorce el gobierno vasco no se niega a dar esa información lo único que hace es

desea toda esa información sobre esa relación de contratos menores ya está disponible ya está disponible y le remite a la web del contrato vasco

yo por cierto antes he hecho el trabajo y he dicho a ver si es verdad esto a ver si funciona esto de verdad y en un minuto

los contratos menores que se pedían aquí desde

aquí todo estado título de contrato adjudicatario importe

y no solo eso sino que además he buscado también los contratos menores desde el uno de enero hasta el día de hoy un minuto un minuto por eso digo que aquí no estamos hablando de transparencia

el parlamento insta al departamento de salud hasta en tanto no se concreten medidas para derogar

como primer paso se busca a través de la tarjeta sanitaria antes de finalizar este periodo de sesiones una medida para facilitar el acceso

el complejo procedimiento aplicado hasta la fecha y se disponga de los medios adecuados para que dicha información sea accesible en los lugares donde se prescriben las recetas y se prescriben

ya existía antes de que el gobierno aprobara el real decreto ley dieciséis barra veinte mil doscientos doce de veinte de

para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones

otra vez hablamos de copago a pesar de que el título de la iniciativa original habla de universalización de las ayudas para la adherencia al tratamiento y facilitación de

interesante y una cuestión además que merece un tratamiento específico en la comisión de salud y en los debates pero como digo

de adherencia a los tratamientos al final de mi intervención sí me centraré en esa cuestión

a través del real decreto ley mencionado

para garantizar la sostenibilidad de la sanidad preservando siempre el derecho a los ciudadanos a la protección a la salud hay que recordar que el sistema sanitario estaba en riesgo

millónes de euros por lo tanto era necesario adoptar medidas para blindar

pública de los efectos de la crisis económica crisis económica que estaba dejando en evidencia o de manifiesto las debilidades y carencias del sistema nacional de salud

el objetivo de las medidas puestas en marcha era mantener y asegurar la sanidad pública uno de los pilares del estado de bienestar y hay que recordar aquí que tenemos una de las sanidades públicas más valoradas por los ciudadanos

de salud a través de este decreto ley los españoles

y se ha establecido un único procedimiento se ha regulado el concepto de asegurado y se definen las posibles situaciones en las que se puede encontrar una persona por lo tanto el avance en la universalización de la asistencia sanitaria pública

claro kopago berri bat ezarri da irizpide berriekin se ha establecido un nuevo copago no se ha establecido un copago ni un repago no es que

por adquirir medicamentos lo que se ha establecido es un nuevo copago en base a unos criterios que han hecho que el sistema sea más justo más solidario y más equitativo porque se han establecido nuevos criterios en base

y a la edad se han corregido a la vez injusticias del anterior sistema aurreko sistemaren hainbat

porque se han incorporado nuevos colectivos como exentos que antes tenían que pagar su parte por las medicinas en concreto

de los medicamentos y con estos nuevos criterios puestos en marcha por el gobierno del partido popular pasan a pagar

por lo tanto se ha tratado de proteger en un escenario de crisis económica a los colectivos más vulnerables a los colectivos que lo estaban pasando peor como pensionistas parados de larga duración como digo que antes no estaban exentos y ahora sí enfermos

el derecho de todos los españoles a una sanidad pública universal gratuita y de calidad máxima erreforma

bermatzea da a raíz

vasco aprobó su propio decreto que fue recurrido por parte del gobierno central que fue suspendido finalmente hemos conocido como no se ha levantado la suspensión de los artículos concretos que se referían a los

del copago farmacéutico por lo tanto también hay que decir que el tribunal constitucional también ha hablado claro en relación a esta cuestión y ha señalado que es una competencia estatal

criterios y en este caso los nuevos criterios en relación a la prestación farmacéutica luego tengo que decir también que todos sabemos las cifras

estas medidas y que a la vez están llevando a poder incorporar y financiar medicamentos más

sistema pero decía que aunque se haya colado y era la intención de esta iniciativa el tema del copago

al asunto concreto de la adherencia porque creo que es un tema importante y

tal y como especifica la organización mundial de la salud estamos hablando del grado en el que los pacientes dan cumplimiento a las instrucciones

enfermedades y que los incumplimientos terapéuticos es una cuestión de trascendencia para la práctica clínica

prevención sino también desde la perspectiva de la intervención una vez detectada a menor adherencia terapéutica peor salud y mayores gastos para el sistema sanitario

celebrada en el mes de noviembre sino recuerdo mal se llegaron a unas conclusiones y se barajaron también unos datos que yo creo que son muy significativos y que los traigo a colación a este debate hay un estudio de la comunidad económica europea

el impacto de la no adherencia a los tratamientos de forma correcta en españa si extrapolamos estos datos hablaríamos de diez mil quinientos millónes de euros y diez mil muertes evitables

en ninguna patología crónica también se concluía que se alcanza el sesenta por ciento de la adherencia o que alrededor del cincuenta por ciento de los pacientes no cumple con las tomas de medicamentos previstos por los especialistas casos de abandono tratamientos

abandonan por encontrarse mejor por lo tanto desde el grupo popular y en ese sentido hemos presentado nuestra enmienda para poner deberes a este ejecutivo

a mejorar la adherencia a los tratamientos prescritos creemos que hay una necesidad de incidir en aquellos factores que llevan al incumplimiento terapéutico como son los efectos secundarios de los medicamentos como es la incomprensión de los mensajes que se dan por parte de los profesionales o el olvido al que antes hacía referencia por lo tanto

los recursos en cada proceso patológico están ahí como son las de estrechar lazos

que se ofrece a los propios pacientes y a sus familiares sobre su enfermedad y controlar periódicamente también el grado de cumplimiento de los tratamientos prescritos

pública que repercute directamente en la calidad de vida de los pacientes y directamente también en el gasto sanitario eso es lo que nosotros hemos plasmado en nuestra enmienda pero vemos que

aquel partido que parece que promulga una vez más la insumisión en un tema muy concreto pues le acompaña el partido

que obviamente no vamos a suscribir creemos que se pide la retirada y la derogación de este real decreto ley

constitucional y que ha mejorado sustancialmente el sistema porque en relación a los nuevos criterios establecidos pues el sistema es más justo más equitativo más solidario se han corregido injusticias

sin prestación tuvieran que pagar el cuarenta por ciento de las medicinas que ahora no pagan

muy solidario tener en cuenta las rentas de las distintas personas a la hora de pagar las medicinas así como también los colectivos que tienen que estar exentos por todo ello

de transacción y defenderemos la enmienda planteada por el grupo popular eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria roncal andrea zurea da hitza

hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley del grupo parlamentario eh bildu

entre los tres grupos que coincidimos en una cosa básica que es en el rechazo al decreto dieciséis barra dos mil doce de medidas llamadas de racionalización y que para todos los demás son de recortes de derechos

que está jurídicamente avalado por el tribunal constitucional pues sepa usted señora garrido que está políticamente rechazado por todos los demás grupos de esta cámara además de toda la oposición en madrid

finalmente llegar a un acuerdo entre los tres grupos pero nosotros insistimos en que hay que utilizar toda nuestra capacidad de autogobierno para hacer frente a esos recortes como ya lo hizo el gobierno de patxi lópez

de toda la oposición en españa oposición política evidentemente señora garrido porque toda la oposición con el psoe a la cabeza se han unido

la anulación de la exclusión de personas por razones administrativas que es lo que supuso la exclusión de quienes están en situación administrativa irregular

con un decreto alternativo y el constitucional nos dio la razón nos dijo

afectaba a la salud de todos y que no suponía el ahorro con el que se quería justificar aquella medida excluyente y de nuevo toda la oposición en españa

se ha comprometido a eliminar también el medicamentazo aquí

y estamos esperando una respuesta del constitucional que todavía no tenemos

es lo que los socialistas promovimos desde el primer momento paliar

consecuencias negativas que tenía ese decreto esta propuesta nuestra aquella que planteaba la compensación y que registramos en diciembre del dos mil doce fue acordada con eh bildu y rechazada por la mayoría de la cámara hoy eh bildu está también con nosotros y en un principio había planteado otra cosa pero hemos conseguido unos mínimos de acuerdo absolutamente no son maximalistas como los que planteaba eh bildu son

y volvemos a coincidir en un acuerdo de nuevo la compensación al copago costó mucho hacer cambiar de opinión al gobierno fue una de nuestras gotas malayas por decirlo de alguna manera ya que por distintas vías tuvimos que insistir hasta que el gobierno ya fuera por las necesidades

e hicimos valer presupuestariamente aquel mandato parlamentario para que no ocurriera lo que ocurre con otros acuerdos de esta cámara que es que

no era nuestro objetivo la compensación generalizada que planteaba bildu

lo que los socialistas queremos es la derogación del decreto dos mil doce ya sabemos que eso no se puede conseguir aquí tiene que ser en el parlamento español esperaremos a noviembre

adaptando la compensación al copago porque como bien se ha recordado por la representante de eh bildu debería llegar a más de medio millón de personas y apenas llega a cien mil nos preocupa que haya personas que en este momento no acceden a las ayudas y que pueden prescindir del medicamento

por eso insistimos en que el departamento de salud debe reforzar la información concreta

en lugar de seguir financiando campañas vacías de compromisos con las personas no los compromisos con las personas

concretar una insistencia nuestra que se recoge en el acuerdo de hoy anticipándonos al debate pendiente en comisión que habíamos planteado adelanto que mantenemos viva nuestra proposición no de ley lo hacemos porque ya realizamos este mandato el pasado año y no hemos constatado el esfuerzo del gobierno así que que sirva de recordatorio que pasado este debate seguiremos recordando

no campañas propagandísticas llenas de buenas palabras y vacías de contenido

también creemos y compartimos con la proponente que hay que simplificar al máximo

que hay que utilizar los sistemas electrónicos para filtrar las personas con derecho a estas ayudas en función de su renta y no obligarlas a hacer papeleos

o cualquier otro método es algo que compete al gobierno y no valen excusas este ejecutivo ha presumido de comunicarse hasta por whatsapp con sus administrados por tanto

para que las personas con dificultades físicas psíquicas o económicas no tengan que perder el tiempo para que les devuelvan lo que es su derecho sean ocho euros u ochenta así que finalmente hemos llegado a un buen acuerdo no es novedoso porque recoge propuestas que ya se han aprobado

por eso es necesario volver a plantearlo la verdad es que inicialmente eh bildu proponía ir más allá

ampliar las ayudas para que nos abonen a los parlamentarios por ejemplo o a personas con recursos que nos devuelvan lo que hayamos podido gastar en farmacia

del derecho de todos a la salud y con ello acceder a las medicinas que se nos hayan prescrito pero no la universalización de ayudas también para quienes no lo necesitamos

no plantea la insumisión señora garrido reitera también el rechazo expreso al decreto que impuso el medicamentazo que parecía que era la preocupación inicial del pnv el rechazo a lo que viene de madrid pues sí compartimos ese rechazo como le he dicho en primer momento pero hay mucho más que hacer aquí y no le veo al grupo parlamentario del pnv el mismo empeño en presionar al señor darpón también nos ha llamado la atención la enmienda del pp

para garantizar la adherencia y aquí ha señalado una serie de factores que pueden interferir en la adherencia al tratamiento todo tipo de razones excepto las económicas ya está bien señora garrido por encima de todo

y directo y que derogue ese decreto lo mismo que ha rectificado en el copago hospitalario

que no haya una sola persona que tenga que pensarse si paga o si adelanta en el caso de euskadi uno euro de la medicina que necesita

que en euskadi también en la álava que él representa en el congreso se está intentando cubrir a las personas

y eso no es un lastre para las arcas públicas es simplemente un derecho

hasta abril de dos mil doce teníamos un sistema sanitario público

el derecho a la protección de la salud de todos anular ese decreto y volver a ese punto sería una rectificación que agradeceríamos todos necesitemos o no acceder a la sanidad pública y hoy es una constatación que aquel decreto de dos mil doce fue

e ineficaz y mientras rajoy siga sin escuchar el gobierno de debe de incrementar su empeño en que nadie quede excluido de su tratamiento farmacológico por razones económicas nada más

bueno pues mire señora roncal y algunos se van a alegrar de su grupo otra vez que nombra al señor zapatero pero uno de los regalitos del anterior presidente del gobierno de españa en cuanto a deuda y a déficit fueron dieciséis mil millónes de euros de

las medidas necesarias para arreglar el desbarajuste que ustedes también dejaron en el sistema nacional de salud

del partido socialista en sanidad y por eso hubo que adoptar medidas medidas valientes pero medidas a la vez y ustedes lo saben muy bien porque conoce

que salvaguardaban los derechos de los más débiles y protegían a las personas mas vulnerables por eso se establecen nuevos criterios en el copago farmacéutico

usted aquí parece que se establece el copago farmacéutico por primera vez

nuevos criterios en base a la renta el grado de enfermedad y la edad de una persona que hacen que el sistema como le digo sea más justo porque acaso no es más justo establecer

a esos pensionistas a los que ustedes por cierto congelaron las pensiones o es que todos los pensionistas tienen que pagar igual es que con ustedes pagaban igual todos los pensionistas y

criterios de progresividad en base al copago para que se pague en función de la renta o acaso es mas justo que los parados de larga duración desempleados con ustedes

pagaban el cuarenta por ciento y ahora no pagan ese cuarenta por ciento por lo tanto es mucho más justo claro que hay personas que pagan algo que antes no pagaban pero en base a la renta en base a la edad y en base al grado de enfermedad que es precisamente además lo que se hace mire miren no se hace un muchos países de europa porque en muchos países de europa que usted además también lo conoce bien se paga por la asistencia sanitaria

por solicitar una prueba diagnóstica por solicitar una consulta de especialista por eso se paga en europa la asistencia sanitaria en españa la asistencia

intentando garantizar este gobierno miren señorías

eso es lo que se tiraba a la basura de medicamentos millónes y millónes de envases sin abrir todos en nuestras casas tenemos

vemos medicamentos caducados y medicamentos sin abrir pues mire también este gobierno lo que ha hecho es prescribir las dosis adecuadas también a los tratamientos que era una cosa que había que hacer y mire por la negligencia

se dejó de aplicar una directiva y de adaptar una directiva a la legislación española y se dejaban de facturar

los años por dar asistencia sanitaria a personas que abusaban de la asistencia sanitaria española porque es que la tarjeta sanitaria confería derechos daba derechos a futuro y por lo tanto una persona con tener simplemente el empadronamiento tenia la tarjeta sanitaria

la pagaba españa y eso no pasa en el resto de los países de la unión europea por lo tanto lo que se ha hecho es una reforma en base a los criterios ya vigentes

mire el auto del tribunal constitucional está el auto

barra dos mil doce de doce de diciembre por el que mantiene la suspensión del artículo ocho

es verdad que inicialmente usted sabe cuando se interpone un recurso de estas características se suspende y se suspendió el artículo ocho pero es que luego hubo un auto que es el que le estoy diciendo que mantiene la suspensión de ese artículo concreto sí que es cierto que levanta otras pero en relación al copago mantiene la suspensión y dice muy clara que es una competencia

competencias injusto ineficaz creo que le he dicho que todo lo contrario más justo más eficaz el ahorro ha permitido financiar nuevos medicamentos incorporar tratamientos innovadores setecientos cincuenta mil tarjetas sanitarias nuevas

españolas que son extranjeras por lo tanto en definitiva un gobierno valiente

de deuda ha adoptado medidas para garantizar la sostenibilidad y viabilidad futura del sistema nacional de salud

ha defendido la insumisión en esta materia yo lamento que un partido que se erige bueno ya no sabemos muchas veces qué defiende el partido socialista en el ámbito estatal pero que es un partido en principio de ámbito estatal

y proclame claramente la insumisión en esta materia como ustedes

pero aquí nadie ha defendido la insumisión nadie ha defendido la insumisión y el grupo parlamentario socialista no ha firmado ningún acuerdo de insumisión porque nosotros creemos que lo democrático es cumplir las leyes

cambiarlas y así le hemos dicho que va a ocurrir después de noviembre cuando haya un cambio de gobierno

del parlamento español ha decidido ha acordado modificar y anular el decreto dieciséis barra dos mil doce ese que según usted

recetaba todos los días miles de fármacos para que se hicieran las casas y hubieran unos botiquines y hubiera que tirar

gastador de farmacia claro que esa farmacia a veces era el gobierno de valencia la comunidad autónoma de valencia

o la de galicia o la de asturias o la de madrid y la de castilla la mancha

de que la sanidad está transferida y que los gastos los hacen los gobiernos de las comunidades autónomas

ahora dice usted que ese decreto que se hizo para sostener el sistema

que le da para financiar los nuevos medicamentos esos por los cuales ha tenido que ser

denunciados en todos los foros jurídicos y políticos posibles por discriminación hacia los colectivos de enfermos no me diga usted

porque ya hemos visto los problemas que se han generado en el colectivo de pacientes y cuánto están penando y cuántos

avanzada están muriendo por no recibir el tratamiento

en fin como digo deseábamos haber llegado a un acuerdo entre los grupos que en esta cámara

por injusto e ineficaz las dos cosas no ha sido posible pero me gustaría interpelar al grupo parlamentario del partido nacionalista vasco porque con las cifras en la mano

para las ayudas a la adherencia del tratamiento solo se gastan diez y porque del colectivo con derecho

algo no se hace bien o algo es susceptible de mejora hay que dar algún paso

no es en la complacencia de que somos los únicos que lo hacemos somos los únicos que compensamos es verdad

pero hay que compensar más hay que compensar mejor y hay que dar pasos para que toda la gente que tiene derecho a estas ayudas

no se queden porque es verdad que estarán en la página web es verdad que

pero la mayoría del colectivo de personas afectadas ni va a zuzenean ni manda por correo electrónico sus demandas

pero para el colectivo al que va dirigido fundamentalmente no es tan fácil y no hay más que mirar los datos

algo hay que hacer para mejorar por tanto decirle que a nosotros también nos preocupa la seguridad jurídica pero habrá que buscar algún sistema algún método para que de quinientos mil puedan acceder quinientos mil nada más muchas gracias

del secretario general para el sahara occidental y además miembro no permanente del consejo de seguridad durante el mandato dos mil quince dos mil dieciséis a

inconcluso desde mil novecientos setenta y cinco mediante la celebración de un referéndum que asegure la expresión

defender la doctrina consolidada de las naciones unidas en materia de descolonización y territorios no autónomos

de la asamblea general de las naciones unidas que instaura el establecimiento de un estado soberano e independiente la libre asociación o integración con un estado independiente con la adquisición de cualquier

por un pueblo constituyen las formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo siendo ese el contenido de la autodeterminación velar en defensa de la paz y los derechos humanos por la atribución a la minurso única

en la protección y promoción de los derechos civiles políticos económicos sociales y culturales de la población saharaui bi